señora presidente desde el escaño el señor maneiro preguntaba en nombre de quien hablaba cuando decía que no nos gustaba el iva cultural bueno pues tengo que

popular vasco que es del que me toca ser portavoz y no no nos gusta

no nos gustan qué le vamos a hacer pero si quiere señor maneiro

me aventuraré y yo creo que a la mayoría del pp nacional

a productos culturales y si quiere que me aventure un poco más

yo creo que el gobierno nosotros creemos que el gobierno va a reducir el tipo del veintiuno por ciento

ya en breve y claro que le animamos señora

y otros muchos que baje este impuesto y otros muchos claro que le animamos hace faltan ánimos señora breñas en todos los aspectos de la vida también en este

por qué terminología utilizamos y es verdad que nosotros

ha evolucionado porque las circunstancias económicas también han evolucionado

es algo más tiene otra dimensión más que la meramente económica eso es cierto y es verdad que los tipos impositivos que se apliquen este y cualquier otro que se aplique a elementos culturales deben de ser muy excepcionales

excepcionalmente protegido por los poderes públicos claro que sí

eran excepcionalmente negativas excepcionalmente preocupantes

y nada más aunque ahora veremos qué es lo que tiene que decir

pero ya me gustaría ya me gustaría que otros grupos parlamentarios cuando han tenido oportunidad

de referirse a medidas políticas del gobierno cuando estaba su partido

hubieran tenido la capacidad y permítame que lo diga la valentía o por lo menos la libertad de criterio para poder redactar enmiendas en este parlamento

cosas como esta por lo tanto espero su intervención

sí señora presidenta es la segunda alusión la partido socialista así que yo sí voy a intervenir de todas formas

ya se que euskadi es diferente pero es usted el partido popular y tiene

al defender que no haya impuestos pero en general

que es tan inconsistente como un palacito que está sujeto por cuatro estacas una crisis social una crisis institucional

y ese palacito está amenazado ya de muerte por un maremoto que viene

que viene de los problemas sociales del sentimiento de la gente que lo pasa mal

eso casa mal con tener que oír que el grupo popular vasco probablemente la mayoría del partido popular piensa que el iva cultural tendría que ser el de antes

bájenlo y ya está es decir no tiene mucho sentido ese discurso porque

lo que se hace y estamos hablando de lo que se hace porque no estamos hablando solo aquí estamos hablando de empresas

de muchos profesionales que están en el paro que ya no tiene paro estamos hablando de eso por

de eso estamos hablando o sea que menos palabras y más hechos aunque solo sea por respeto

ese es el asunto mire cuando llegaron ustedes al gobierno había una deuda como siempre hay en un estado había un déficit público sabe usted que ahora la deuda

tres años después prácticamente la deuda es todo lo que puede producir toda la riqueza del país en un año veintinueve puntos más que en tres años qué han arreglado si es veintinueve puntos mayor sabe que tenemos el segundo mayor déficit público en porcentaje de pib de los países más desarrollados

aparte de destrozar derechos básicos y de que aumente el paro

porque si usted hablara solo del iva cultural yo le hablaría solo del iva cultural pero dicen

a que continúe bajando impuestos t que no le gustan los impuestos entonces le gusta

porque sin impuestos no existe nada de eso solo para los que lo puedan pagar

ultraliberal de sálvese quien pueda pero eso es muy difícil de compartir y es difícil que en esta época en un estado social y de derecho

lo diga alguien que no le gustan los impuestos en cualquier caso mire para rematar pongo algún dato más

que no les gustan los impuestos y que animan quiere que animemos a bajar a su gobierno han hecho ustedes la mayor subida de impuestos de la democracia de esta democracia

de números y han hecho ahora una reforma de impuestos

el día uno de este año que beneficia claramente a las rentas más altas a las grandes corporaciones y que además tiene un coste recaudatorio

si tenemos el déficit público que le acabo de decir la deuda pública si es que

con qué vamos a pagar los servicios públicos

que pagamos todos que no son progresivos porque los otros ya los han modificado para beneficiar

euros y el diez por ciento de los contribuyentes se beneficia de la mitad de ese coste fiscal que es coste porque es lo que se deja de recaudar

si hablara usteddel iva cultural que tampoco lo han beneficiado gracias eskerrik asko reyes jauna

señor maneiro cómo que no vemos cuestiones positivas en las propuestas de los demás grupos

ya lo hicimos el año dos mil trece la propuesta fue la que salió fue la que presentaron el partido socialista que apoyaron ustedes

y hoy hemos hecho exactamente la misma he comenzado diciendo que en lo que es espíritu de la propuesta que hacían ustedes estábamos de acuerdo

elegido un camino que sabían de inicio no llevaba a ningún lugar que no llevaba a ningún lado por eso he dicho lo que he dicho y usted entiendo muy bien luego ya lo ha tergiversado nos habla de la fiscalidad única europea oiga a fiscalidad única europea

si es con la española y es incompatible si la tenemos nosotros la compatibilidad será exactamente la misma pero por qué la queremos nosotros

que nosotros lo hacemos mucho mejor cuando tenemos las competencias señor maneiro y no entiendo por qué usted no apoya eso apoyar eso es apoyar a la ciudadanía vasca y usted que se nombra o auto denomina defensor de la ciudadanía vasca casi único pues me extraña mucho que no busque esto para la ciudadanía vasca

esto es el pan nuestro de cada día es decirle al gobierno vasco

a lo que hace mal el gobierno de españa y lo hacen en todos los ámbitos

claro lo que no cuentan es que el gobierno vasco no tiene

porque está condicionado por una legislación básica

que es de obligado cumplimiento y ustedes lo saben pero claro es muy fácil pedir

con esas cosas mire hoy mismo he escuchado en la radio a un representante sindical para justificar una huelga que no era

la legalidad impuestas por la legislación española porque la

claro para llegar a un acuerdo las partes tienen que querer ambas partes no solamente una parte con lo cual eso es a lo que nos está llevando el postureo que ustedes hacen en esta cámara un día sí y otro también mire el único modo

y sus invasiones competenciales es que no puedan hacer ni legislación básica ni orgánica y que el tribunal constitucional

sin límites para ello es imprescindible un cambio de status todo lo demás es poner parches

y electorales por eso necesitamos nosotros las competencias
para hacer mejor la vida de la ciudadanía vasca muchas gracias eskerrik asko

que una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer hoy asistimos a una verdadera crisis histórica

las crisis suelen decirse que son la mayor oportunidad para el cambio para romper con lo viejo y avanzar hacia una nueva realidad esta reflexión es válida para analizar la realidad actual de europa

donde hay dos paradigmas enfrentados uno la defensa de la democracia representada hoy básicamente por grecia y dos una defensa de los intereses de la élite económico financiera que no olvidemos

a la realidad que conocemos o que conocimos anteriormente al estallido de la crisis así podemos definir que existen tres fuerzas enfrentadas actualmente el viejo modelo europeo del estado del bienestar que es el que está muriendo y dos nuevos modelos que pugnan por la hegemonía histórica la democracia

no a las instituciones políticas supranacionales sino a las entidades financieras internacionales

al pueblo griego y no al uno por ciento de sus multimillónarios y así ha puesto en marcha lo que se ha definido como el plan de reconstrucción nacional que tiene cuatro bases enfrentar la crisis humanitaria el segundo relanzar la economía y promover la justicia fiscal tercero recuperar el empleo

de dicho plan y contra viento y marea ya ha aumentado el salario mínimo interprofesional vuelve a pagar las pensiones a los pensionistas y ahora se plantea hacer una auditoría de la deuda griega para conocer si existe deuda que no debe ser pagada por su carácter ilegítimo

y pretenden presionar al gobierno legítimo griego para que no cumpla sus medidas y continúe aplicando al pueblo griego las políticas asesinas de la troika la semana pasada tuvimos la suerte de contar entre nosotros con el recién nombrado coordinador

que nos dio las claves de la auditoría y se refirió a que esta sería justa e incluso vigilaría

una auditoría de la deuda para cualquier administración pública transparencia

y soberanía los acreedores no pueden fijar de ninguna de las maneras la actividad política de un estado y menos socavar su capacidad ejecutiva

aunque no lo olvidemos primero grecia quiere pagar aquello que debe pagar y segundo está cumpliendo con la normativa europea

la obligación de realizarla digo la auditoria se fija en el reglamento cuatrocientos setenta y dos referido

a asistencia financiera en el artículo siete punto nueve se dice tal cual

identificar posibles irregularidades y todo esto hace temblar las estructuras económicas mundiales pues sí

la defensa del estado del bienestar y de los derechos sociales laborales y económicos de la ciudadanía asusta mucho a los mercados pero por qué

del pueblo de las políticas que determinan sus vidas menor será la capacidad de los mercados de continuar el expolio que perpetran contra la ciudadanía mundial

de la unión europea definidos en sus principios fundamentales y leo textualmente los valores de la unión la unión está fundada sobre los valores de respeto

democracia igualdad estado de derecho y respeto a los derechos humanos incluidos los de las minorías esos valores que se anuncian en el artículo uno y dos son comunes a los estados miembros además

la no discriminación la tolerancia la justicia la solidaridad y la igualdad entre

una vez leído cuáles son los valores de la unión alguien aquí presente puede decir que la actual europa defiende esos valores o más bien defiende los intereses de los acreedores de grecia

fue el que llegó finalmente al pueblo griego ya que el resto sirvió para pagar directamente a los bancos acreedores fundamentalmente oh sorpresa alemanes y franceses

el programa electoral de syriza créanme no es un programa de izquierda revolucionaria más bien es un programa

quiere reconquistar los espacios de la democracia que han sido usurpados por parte de los mercados y de los mercaderes quiere recuperar los espacios

por el capital y los capitalistas con un objetivo darle un futuro

europa en su conjunto asiste a un cambio de rumbo o más democracia

día a día se demuestra que ambos conceptos son incompatibles los intereses de la banca y el capital no pueden estar superpuestos a los intereses legítimos de los pueblos el futuro no puede quedar hipotecado bajo la losa de la deuda los derechos sociales económicos y políticos de los pueblos deben prevalecer y ser hegemónicos frente a la dictadura de los mercados y sus intereses

hoy el fantasma que recorre europa es un fantasma con una guadaña en su mano que nos depara para el resto de los países de la periferia europea la misma pesadilla que hoy vive

que se base en la solidaridad el internacionalismo y la justicia

no cabe otra opción que la de apoyar esta propuesta que presentamos hoy aquí para su debate y demostrar así al pueblo griego que no está solo en su lucha a favor de la dignidad
y la vida digna una vida que merezca la pena ser vivida como ciudadanos libres y no como esclavos eskerrik asko lópez de munain jauna

pudor y tener que posicionarme en relación a esta iniciativa y desde upyd tener que decir a los griegos qué es exactamente lo que tienen que hacer me da ciertamente mucho pudor aparte de trabajo yo en fin bastante tengo con controlar la acción del gobierno vasco

lo que hace el gobierno de españa como para tener que dedicarme también a controlar qué es lo que cada uno de los ciudadanos europeos decide allí donde vive y tener que decir en este caso

aquí lo que se propone básicamente es que nosotros apoyemos la vía emprendida por el gobierno de grecia que respetemos la decisión adoptada por el pueblo griego

y nosotros no vamos lógicamente a hacer nada de esto nosotros sí respetamos las decisiones tomadas por los griegos pero ciertamente no vamos a

no digo que no sea un asunto relevante importante

al conjunto de la ciudadanía europea y por lo tanto también a los vascos pero ya digo que es una iniciativa que me produce pudor

si el camino emprendido por ellos es el correcto o no o qué es exactamente lo que tienen que hacer por lo tanto nosotros vamos a votar en contra de esta iniciativa y vamos a apoyar nuestra enmienda de totalidad si me apuran yo puedo darles humildemente algunos consejos a los griegos sobre qué es lo que pienso yo desde la distancia

yo creo por lo que he visto y he escuchado que lo que los griegos deberían hacer es impulsar todas las reformas administrativas que sean necesarias para modernizar su administración

elegido democráticamente sería modificar o corregir todas las estructuras que están a día vigentes hoy en ese lugar y desde luego modernizarlas

evitar el despilfarro y evitar gastar aquello que no tienen

es corregir la mala gestión llevada a cabo por gobiernos anteriores y luchar contundentemente contra la corrupción porque creo que estos

durante los últimos años y creo que estos son los cambios que ellos deberían impulsar pero ya digo lo digo con toda la humildad del mundo también creo que deberían hacer frente por lo tanto aparte de estos problemas

y deberían pagar la deuda y creo que también los europeos deberíamos ayudarles a los griegos

estas decisiones por el bien de los propios griegos y por el bien del conjunto de los ciudadanos europeos yo esto es lo que soy capaz de decir en relación a esta cuestión yo en fin animaría a los griegos a votar a upyd en las próximas elecciones pero de momento hemos decidido que allí

por lo tanto no tendrán esa opción en todo caso que analicen cuáles son los problemas que tienen

y que sean exigentes con su gobierno esto es lo que yo tengo que decir y efectivamente el resto de los ciudadanos europeos lo que yo creo que tenemos que hacer es

las mejores decisiones para que salgan de la situación en la que se encuentran no creo que tengamos que ponerles obstáculos algunos han pretendido hacerlo

sino todo lo contrario ayudarles a transitar ese camino

de totalidad nosotros proponemos instar el gobierno de grecia al gobierno de españa y a las instituciones europeas

inteligencia buena fe y ánimo constructivo para que cuanto antes sean capaces de alcanzar los acuerdos necesarios que mejoren el bienestar del conjunto de los ciudadanos europeos y proponemos instar a los gobiernos a las instituciones de europa al gobierno de españa y especialmente al gobierno vasco puesto que estamos en euskadi

y con contundencia la pobreza la precariedad laboral

y el desempleo que sufren miles de ciudadanos porque efectivamente esos son los principales problemas que sufrimos el conjunto de la ciudadanía esta es por lo tanto
la enmienda de totalidad que hemos planteado gracias eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta el discurso que nos ha hecho era previsible la demagogia habitual pero yo por centrar un poco y para hablar de verdad de los griegos le diré que el problema de grecia

paga el tipo de interés más bajo de toda europa desde el dos mil trece

hoy en el cero coma nada por lo tanto el tipo de interés de la deuda griega no es el problema el plazo para devolver

hasta cincuenta años con una quita de diez años por lo tanto ese tampoco es el problema no es el problema usted habla de los mercados la banca tal y además últimamente se compara mucho

todo eso supuso el veinte por ciento del pib de alemania en aquella época

le hizo a grecia en el dos mil doce que fue del setenta y cinco por ciento de su deuda

la privada la de los bancos esos que usted dice y que critica tanto el setenta y cinco por ciento

con los países europeos ha supuesto ya el setenta y seis por ciento

eso hoy y yo no sé si

exactamente cuál la finalidad de traernos

el de los griegos de verdad pues mira le podría decir que han tenido la mala suerte de que el gobierno que estaba haciendo las cosas para poder salir no tenía mayoría absoluta y como no tenía mayoría absoluta se han dedicado a hacer demagogia todos los demás se lo han cargado y ahora

pues como los españoles votaron bien no ha ocurrido y por eso nosotros no estamos en el rescate y por eso le dije en la comisión que ya sentía defraudarle pero españa ya no está en quiebra

su economía o la falta de ella es decir cuando usted tiene que devolver un prestamos al cero por ciento tiene una quita de diez años

que no tiene ingresos ese es el problema que no tienen ingresos que no tienen ingresos fiscales

que no tienen ingresos para pagar y qué otro problema tienen usted que habla de los mercados mire tienen

nadie de esos mercados les presta nada porque es deuda basura le prestamos

los ciudadanos europeos por ese artículo que ha leído usted de la solidaridad en europa ese no son los mercados

ninguno su problema cuál es que necesitan superávit fiscal para tener superávit fiscal generar ingresos en impuestos

tiene que ser productiva tiene que ser un país que cree condiciones para que las empresas inviertan que se creen puestos de trabajo que la gente pague impuestos se recaude y sabe cuál es el problema de grecia hoy que es el que programa de syriza que tanto le gusta a usted

porque el programa es más gasto público más empleos públicos

y para pagar eso y los ingresos de dónde salen

en estos últimos cuatro años y usted nos habla del señor

compareció aquí la semana pasada y le pudimos hacer preguntas y yo le hice algunas lo que pasa es que no me contestó a alguna de ellas

que el dinero que los griegos nos deben a los españoles por ejemplo por el prestamos que les hemos dado con el resto de países europeos

y que por lo tanto los griegos no tienen porqué devolverlo para acto seguido decirnos que oiga que todavía nos tienen que dar más dinero que no han cumplido todo oiga pero es legal es ilegal pero qué juego es este

por qué no contestó a eso si es ilegal por qué le tenemos que dar más dinero a grecia porque si es ilegal lo que tendremos que exigirle a los gobiernos de españa de francia y de alemania oiga ni un euro más y que nos repongan ipso facto el dinero que les hemos dado

yo mire solo con lo que nos deben a nosotros es superior a lo que ha costado el rescate de bankia que en fin pagamos más intereses que los que pagan los griegos

a lo mejor no tendríamos que haber pedido prestamos para rescatar por ejemplo a bankia

sino a los depositantes y a los ahorradores los dueños los accionistas desaparecieron todos y si ustedes

que una política fantástica es no pagar las deudas yo se lo dije ya hace tiempo a ustedes

no paguen sus deudas que la diputación de gipuzkoa no pague sus deudas

de esta iniciativa no termino de ver cuál es el fundamento de la exaltación de esta adhesión al gobierno de grecia y este tratamiento que se le da a la iniciativa para casi convertir al gobierno de grecia como el símbolo de la gobernabilidad

el gran gobierno europeo como no termino de ver también qué es una negociación de buena fe entiendo lo que es una sociedad recorrida por intereses contrapuestos entiendo lo que es una sociedad plural entiendo lo que es unan negociación entre diferentes entiendo lo que es una negociación con objetivos una negociación con resultados

a la unión europea sin embargo esta iniciativa no se mueve por estos parámetros de entendimiento sino por una

en un tiempo en el que el gobierno de grecia no termina de aclarar además qué quiere hacer con grecia quizás lo tenga muy claro bildu pero desde luego no lo tenemos claro nosotros

poner en claro cuál es la relación que quiere tener con la unión europea quizás lo tenga claro bildu no lo tenemos nosotros y también somos parte de esa unión europea

cuál es la viabilidad de sus propuestas económicas y sociales porque también está obligado a explicar la viabilidad de sus propuestas económicas y sociales

el actual gobierno de grecia que tiene obviamente todo nuestro respeto democrático desde luego no es nuestro referente si de lo que se trataba con esta iniciativa es decir que es el referente de bildu

pero no es nuestro referente un gobierno compuesto por la coalición de la izquierda radical por syriza y por independentistas conservadores

es un gobierno sustentado en ideologías tan contradictorias que no merece

absoluta tal como se nos propone por citar solo dos diferencias ideológicas con un componente de ese gobierno señalaré que anel es contrario a la educación laica y también

pero añadiré más no comparto que la coalición de gobierno considere oportuno y así lo ha pactado para poder formar gobierno que no se separe la iglesia del estado

más altos del mundo y a la vez una situación social de su ciudadanía altamente dramática

que grecia es una realidad plural sujeta a diferencias e intereses variados y la unión europea otra como lo es españa o como lo es francia y que ningún gobierno

en su totalidad esa pluralidad esas diferencias y esos intereses variados que a su vez configuran las sociedades democráticas por lo que ningún gobierno

absoluta como se ha planteado grecia tiene su soberanía y su propio camino y los demás países de la unión europea también y además hay un espacio común la unión europea donde es evidente que hay enormes desigualdades

y muchos intereses contrapuestos querer aplicar a esta realidad es un pensamiento único una propuesta única no entiendo a qué reflexión política obedece y desde luego no es a la nuestra los socialistas vascos podemos compartir y compartir con quien así lo quiera que europa retos de primera necesidad tanto para la convivencia como para la solidaridad como para la igualdad como para la justicia social retos como proteger a los países con economías en crisis la nuestra también lo es de los especuladores

retos como dar otro tratamiento a la deuda acumulada que evidentemente en algunos casos es absolutamente imposible a ella y que también tienen responsabilidad y deben de asumir

aquellos que quisieron hacer negocio con ese dinero prestado tenemos retos como favorecer la liquidez de los países para atender necesidades ciudadanas algo que todavía no sucede adecuadamente tenemos retos como acabar con los paraísos fiscales y sus sucedáneos

con contundencia el fraude fiscal que todavía no se persigue para garantizar la relación económica del banco central europeo con los estados de la unión que todavía no se produce para proteger constitucionalmente en el ámbito de europa un espacio social común de derechos en educación en salud y en atención social

al pleno empleo como objetivo número uno tenemos también el reto de implantar una política pública redistributiva que recupere igualdad entre las personas

la situación política y económica de la unión europea requiere de muchos cambios y de otras políticas alternativas a las actuales

en este sentido trabajamos todos los días en las instituciones de nuestro país y también en el parlamento europeo todo nuestro respeto para la ciudadanía griega

toda nuestra determinación para recuperar igualdad y solidaridad y también

a esta iniciativa por proponer una adhesión que es de todo punto de vista político ilógica e inexplicable muchas gracias eskerrik asko

errikos finalis miembro del comité central de syriza se reúne con rebeca ubera eta egun hartan bertan

la parlamentaria ha advertido de que las medidas de austeridad impuestas a grecia son muy similares a los recortes aplicados en euskadi en sanidad políticas sociales empleo y educación

de intentar hacer el debate a llevarlo a términos cómicos el que no quieren pagar la deuda o que volvemos a repetir una y otra vez que el gobierno de syriza está apoyado

en relación a lo que quieren o no quieren pagar la deuda yo creo que usted no me ha entendido o no me ha escuchado evidentemente que quieren pagar la deuda así lo han dicho además lo que están haciendo de qué deuda es legítima y cuál no deben pagarla porque no la debería pagar absolutamente nadie le voy a poner un ejemplo la comunidad de madrid una obra en madrid le costó a la administración pública más de cien millónes de euros

el que tiene que alquilar para la utilización de esa obra esos cien millónes de euros que costaron es una deuda legítima porque se ha privatizado una obra que fue pagada con dinero público

también se ha hablado de que si el gobierno de syriza no se le puede apoyar porque están apoyado por la derecha hombre

porque los diferentes gobiernos del pasok o no ha apoyado el propio pasok

sería decir poco cuando ha sido el propio pasok el que uno fue uno de los

nos referimos a los gastos militares habría que recordar también que es una de las condiciones sine qua non que se le impone al gobierno griego

para seguir recibiendo inversiones tanto americanas como europeas y es una de las condiciones que se le ponen hoy por hoy también encima de la mesa

que a grecia se le puedan aplicar esa serie de indicaciones a la hora de tener que afrontar

ustedes dicen que no defenderán grecia lo entiendo ustedes hace tiempo

solidaridad y justicia evidentemente no pueden apoyar a ningún gobierno que pretenda ser absolutamente democrático y defender los intereses

son responsables también de ese cambio en la constitución española

agosto en el que lo que se primaba por encima de los derechos de la ciudadanía es pagar la deuda esa misma deuda odiosa que hoy quieren quitarse también o pretenden quitarse grecia para poder

los intereses de la ciudadanía por encima de los intereses de los mercados pero es que también habría que recordar que grecia debe al estado español en sí en esencia

eso es cierto debe también grecia pero ya no al estado español debe

a las entidades financieras o especuladores de origen español

pero lo que no dice el gobierno español es que esa deuda también está avalada por el propio estado español y que en caso que no la pague grecia

eso no es culpa de grecia y si grecia admite que esa deuda no es legítima porque es en base a especuladores privados del gobierno españo l que por los índices o el índice al que se paga el interés

eso es problema de los inversores el problema es que ustedes defienden ese capitalismo de amiguetes

el que pierde siempre es la administración pública porque ustedes y los suyos no pierden nunca porque para eso está detrás el papa estado para pagarles lo que ustedes han invertido o todo el dinero que quieren ganar ese es su problema se ha hablado también de cuál es el modelo o cómo europa o a quién debe dinero realmente grecia el problema en europa es que el banco central europeo que es al que todos los estados ceden su dinero

no da directamente a los estados el dinero lo da a través de las entidades privadas entidades financieras privadas y ese cambio también lo aprobaron ustedes

a los bancos a controlar el dinero público de todos los europeos y eso lo hicieron ustedes también en europa esa europa del capital esa europa tan buena de todos los derechos y libertades esa europa lo único que defiende una y otra vez son los derechos y las libertades de las entidades financieras o los intereses de los bancos el propio juncker que creo que no será un defensor acérrimo

atentó contra la dignidad de grecia portugal e irlanda durante la gestión de la crisis

democrática ustedes les dan esa legitimidad democrática ustedes están avalando las políticas europeas defendiendo una y otra vez a los acreedores por encima de los pueblos ustedes el día que y eso no estoy tan seguro señor damborenea que el estado español no sea un estado en quiebra
el día que vuelvan a pasar o que vuelvan a exigir al estado español amaitzen joan mayor compromiso

a favor de la banca ustedes se pondrán a favor de los acreedores y no de la ciudadanía y ese es el mayor de los problemas ustedes representan también en esta institución los intereses de los mercaderes y de los mercados y otros pretendemos representar la dignidad de los pueblos
la libertad la solidaridad y la justicia eskerrik asko

y nosotros respetamos lo que han votado ahora al gobierno que tienen al anterior al anterior al anterior y al anterior porque es lo que han votado los griegos

los gobiernos griegos llevan sus presupuestos al parlamento griego se aprueban con la deuda los ingresos los gastos etcétera etcétera como está haciendo syriza hoy si es que lo está haciendo si es que lo está haciendo porque a mí no me consta que haya presentado ningún proyecto de presupuestos supongo que en algún momento lo hará nosotros eso lo respetamos

que aquí hay gente que se le llena la boca de democracia y democracia y solo es democracia lo que él dice

lo que ellos decían era muy democrático porque los demás no opinan

y no es obligatorio estar en el euro no es obligatorio

hay unas reglas y unos socios y los griegos pueden votar lo que quieran y los alemanes lo que quieran y los franceses lo que quieran y los españoles lo que quieran faltaría más mire usted

falta tener cuajo para decirnos claro es que a los españoles nos deben y digo a los españoles porque somos los que pagamos con nuestros impuestos

de la banca oiga claro se lo he dicho antes sí la banca privada

del setenta y cinco por ciento al estado griego en dos mil doce forzados evidentemente por los estados miembros

que se comprometieron además a prestar y fue el rescate de grecia

y esto es la solidaridad de los ciudadanos europeos con un país europeo con muchos problemas si hoy tienen sanidad

si tienen es porque la pagamos los europeos si tienen educación hoy es porque pagamos los europeos

es porque no tienen ingresos suficientes para pagarse ellos eso se lo he dicho desde el principio que el problema no es la deuda que tienen que pagarla dentro de cincuenta años que no son los intereses

que no nos venga aquí a hacer demagogia con estas cosas y yo le repito yo no sé usted qué concepto tiene de europa

los demás no pueden opinar tienen que hacer todos lo que diga el gobierno griego porque es el que a usted le gusta usted me está diciendo

mire no sé ya ni lo que plantea pero creo que usted tampoco

saben que se han metido en un lío con una campaña electoral diciendo unas cosas

nadie les da un duro y que usted nos venga hoy a decir todavía que es que los estados

a grecia es ilegal por lo tanto no tiene que pagarlo pero por favor dennos más que todavía se comprometieron a dar más

ustedes y los que plantean eso que casualmente no es ningún griego

las cosas que nos dijo en la comisión el otro día y usted

gran cosa que decir después de escuchar la segunda intervención del portavoz de euskal herria bildu

no debería hacerlo cómo llevan a gala una visión tan sectaria tan sectaria de la política y por añadidura de lo que debería de ser la vida cuando menos democrática hacen ustedes loas a la democracia

y dentro de la cuadrícula que a ustedes les gusta todo lo que se sale de la baldosa que ustedes ocupan o de algo que les parezca muy similar o que les guste por la razón que sea en un momento determinado todo lo demás

upyd aurkeztu duen zuzenketari ere ezezkoa emango diogu porque no nos vamos a privar de hacer soflamas nacionalistas tampoco en este punto señor maneiro ya lo siento

de turno durante estos últimos treinta y cinco años para ir laminando las competencias que legítimamente nos corresponden no que nos correspondían no que nos corresponderían sino que nos corresponden en base a ese estatuto de gernika que ustedes sobre todo ustedes los de ahí enfrente una y otra vez dicen que es punto de encuentro de todos

pues si son pocas las excusas yo que sé la legislación básica o las sentencias de determinados tribunales de altas instancias esto de dejarnos aparte de los ámbitos de debate que nos corresponderían según nuestras competencias propias según el estatuto también en europa

involución centralizadora uniformizadora del estado español honekin bukatu dut eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea

mi grupo parlamentario los socialistas vascos traemos a este pleno

y un mandato parlamentario que como tantos otros parece que como dijo el lehendakari lo toman como orientación pero no como la voluntad mayoritaria de quienes representamos a los vascos las vascas y es verdad hace diez días el gobierno

un borrador en la línea planteada exactamente un año antes un borrador que para convertirse en plan efectivo necesita del concurso de quienes van a verse afectados por el plan de empleo de la administración general de euskadi por eso en aquel mandato hablamos de consenso pero no apunta a que vaya a ser así y mucho nos tememos que este plan quede

de todos los que acostumbran a presentar este gobierno he repasado de donde viene este plan y me he remitido a la pregunta que se realizó mi grupo

al señor erkoreka en noviembre del dos mil trece en la misma formulación de la pregunta idoia mendia ofrecía el diagnóstico lo hacía porque el anterior gobierno ya se planteó la preocupación entorno al envejecimiento

que realizaron los propios servicios del departamento por cierto también con la variable de género por mucho que ahora se nos presente como novedoso

la existencia de ese diagnóstico porque completó

según se constata en esta respuesta ante el parlamento en noviembre del dos mil trece el diagnóstico ya estaba hecho

actuar desde el diagnóstico pero siguiendo en esa misma intervención

que no era un asunto perentorio ni angustioso informó de la constitución de un grupo de trabajo y cinco meses después

el grupo del pnv aceptó nuestro criterio de elaborar el plan de empleo consensuado que garantizara el relevo generacional

un año después no hay plan hay un nuevo diagnóstico el borrador de ese plan y se proponen dentro del mismo medidas pero no se explica

lo que la señora mendia auguraba en noviembre del dos mil trece que se puede acabar en la parálisis por el análisis ya tienen ustedes un nuevo análisis y ahora qué lo han trasladado a la mesa general el pnv proponía

pero este gobierno confunde el diálogo con el acuerdo

tiene un serio problema para lograr acuerdos con los trabajadores públicos los socialistas somos extremadamente respetuosos con las negociaciones laborales

es una constatación evidente y así lo explican todos y cada uno de los sindicatos en las mesas negociadoras que el gobierno

y no se esfuerza verdaderamente en negociar y acordar podemos volver a citar todos los frentes abiertos la rpt de lanbide los planes de la ertzaintza el ere en eusko irratia

en una movilización compartida y podemos volver a repetir lo que se nos ha escuchado ya de forma reiterada en esta cámara ustedes presumen

también presumen de discrepancias pero también de acuerdos pero no ha habido un esfuerzo no ha habido ningún esfuerzo por mejorar las tasas de reposición

duplica a la media de la administración del estado en la pasada legislatura se hizo y eso permitió que se celebraran

para mejorar la estabilidad de las plantillas que deben de garantizar la prestación de estos servicios públicos en esta legislatura sin embargo que tenemos las ope aprobadas son limitadas son escasas

dictaminado por los presupuestos generales del estado pero sin un esfuerzo adicional no ha habido interés en seguir la senda de reducir la interinidad es más la única convocatoria de empleo

ha sido para dar cobertura a un ere que destruye empleo en eusko irratia por eso creemos

con apelar a una mesa de diálogo hay que apelar al acuerdo y el acuerdo

porque tiene la responsabilidad de garantizar el servicio público es decir le corresponde a la administración le corresponde al gobierno vasco por eso creemos

plazos porque a estas alturas de la legislatura ya no valen planes genéricos que no se fijen objetivos en el tiempo por otro lado creemos también que se debe establecer un calendario de ope porque no vale anunciar una intención en un consejo de gobierno

sin buscar consensos reales dentro de las mismas y perderse en el tiempo sin que nada se materialice y quiero recordar el mandato expreso e incumplido

expresamente el grupo que apoya al gobierno y que decía literalmente así el parlamento vasco insta al gobierno vasco a elaborar un plan de empleo para la administración vasca que diseñe la organización

respondiendo las necesidades de demanda de servicios actuales y garantizando por medio de una meditada y consensuada planificación

y analizar dentro del marco normativo vigente la posibilidad de convocar ope en el mismo año dos mil catorce en septiembre del año pasado en el pleno de política general le preguntamos por ello al gobierno lo hemos hecho también con posterioridad en plenos de control y un año después

tenemos un borrador con un diagnóstico y propuestas sin objetivos estamos muy preocupados con su concepto de lo público estamos

que no entienden que son los empleados públicos los que garantizan los servicios públicos estamos preocupados porque se sientan ante los sindicatos como gerentes empresariales pero no como garantes de los derechos ciudadanos de esos servicios por eso hoy queremos renovar el anterior mandato el mandato que se firmó ya aquí hace un año pero

antes de fin de este periodo de sesiones deberemos de contar con un plan de empleo de la administración general de euskadi y también con un calendario de ope esa estabilidad de las plantillas también con un método y les pedimos que negocien con los sindicatos

se haga un mero paripé de negociación sino que se busque verdaderamente el acuerdo no se haga ese mero diálogo sino que se busque el consenso y también

y garantizar la prestación de los servicios públicos desde criterios de eficiencia adaptada a las necesidades de los ciudadanos con empleados públicos con condiciones laborales y salariales dignas y estables bien formados y preparados

a los retos actuales y futuros hay que rejuvenecer la plantilla y consolidar los puestos interinos evitando la descapitalización del personal eventual conseguir la igualdad

a las necesidades derivadas de las nuevas tecnologías y las demandas de la administración pública electrónica nuestra iniciativa se presentó de este año con posterioridad hace diez días se ha presentado el borrador y llevado a la mesa sectorial de la administración general del estado

transaccional la que defiendo hoy aquí y que doy las gracias a los grupos que la han firmado al grupo nacionalista

porque creo que se consigue un avance porque no solamente se pide que se haga sino que dentro de esta enmienda transaccional se marca y dice literalmente la misma que el parlamento vasco

presente en la cámara un plan de empleo y un calendario

de ofertas públicas de empleo para el conjunto del sector público negociados con los representantes de los trabajadores a fin de garantizar el indispensable relevo generacional

desde criterios de eficiencia adaptada a las necesidades de los ciudadanos con empleados públicos con condiciones laborales y salariales dignas y estables

actuales y futuros al grupo eh bildu que es el único

decirles que siento que no se sumen a este acuerdo porque yo creo que en estos momentos es vital marcar un plazo para que el gobierno vasco tenga ese plazo como tope y que además va a venir a coincidir con el plazo de otro mandato recientemente aprobado aquí

se pedía que la ley de empleo público viniera a este parlamento antes de finalización también de este periodo de sesiones también negociada

representantes sindicales por tanto todavía están a tiempo de sumarse aunque no la han firmado a esta enmienda transaccional porque yo creo que a estas alturas de legislatura como he señalado es importante también marcar un plazo

muchas gracias señora presidenta señores y señoras parlamentarios

es amplio y la señora sánchez también ha explicado el contenido del mismo nosotros estábamos a favor de la propuesta inicial por supuesto hemos buscado la transacción y esperamos ahora y la hemos firmado efectivamente y yo creo que como ella ha dicho es un avance

gobierno actúe en relación con la negociación del plan que el gobierno también ha aprobado en forma de borrador o de propuesta pero

como he dicho antes estaba bien la propuesta inicial pero también es necesario y nosotros

que habría que instar también a los propios sindicatos a que hagan todo lo posible por ayudar a la administración y por colaborar

constructivo en el aspecto negociador de todas estas cuestiones de las que estamos hablando yo creo que no está de más de más hacerlo sobre todo en un día de huelga en este caso

en osakidetza de un día de huelga como hoy huelga que es una mala noticia para el país por eso yo creo que también

a los sindicatos y es lo que pretendíamos nosotros filosóficamente puede estar recogido

a los representantes de los trabajadores de la administración pública vasca a que en consecución

y objetividad en la negociación realismo y objetividad que muchas veces

la enmienda de transacción recoge tres elementos básicos fundamentales en relación con el proceso de todo este debate de esta cuestión que se da un plazo actual periodo de sesiones para que se presente a esta cámara el plan de empleo público un calendario una segunda de las cuestiones de convocatorias de ofertas de empleo para el conjunto del sector público y desde luego el elemento básico el elemento fundamental e importante pues esa

trabajadores en busca de los acuerdos pero cuando menos la negociación a lo que hay que instar en este momento al gobierno ya que tiene un instrumento para

la disposición de los representantes de los trabajadores algunos de ellos algunos de ellos

concentrados en soflamas políticas que en intereses laborales el gobierno nos presentaba un primer plan de empleo

sus planteamientos la foto fija del plan evidencia una plantilla media de cincuenta coma ocho años que se jubilarán en un sesenta por ciento antes del

el plan detecta desigualdades de género el gobierno

interinos evitando la descapitalización alcanzar la igualdad de género adecuar los puestos de trabajo a las necesidades de una nueva administración pública electrónica bueno ahí están los objetivos las grandes líneas vamos a ver qué pasa los

rejuvenecimiento de la plantilla concursos de traslados procesos especiales de consolidación oferta pública de empleo un segundo grupo esa adecuación de la estructura organizativa elemento fundamental por otro lado y ese tercer elemento del que hablábamos antes

qué nos envía el gobierno en cualquier caso yo creo que el acuerdo es amplio el acuerdo es un avance en ese sentido mi grupo votará a favor y

y del desarrollo de las negociaciones y del desarrollo del documento por parte del gobierno muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

zurea da hitza sí gracias presidenta únicamente para decir que votaré a favor de la transaccional que he firmado gracias

a una interpelación de finales del año pasado confirmó que ya se está trabajando

reorganización o redimensionamiento de la administración al objeto de prever las insuficiencias que puedan existir en un futuro y poder darles respuesta adecuadamente

la existencia de un grupo de trabajo para desarrollar

básico del empleo público y en relación con la planificación de los recursos humanos y la posibilidad de aprobar planes para la ordenación de los mismos y así se ha hecho este plan cumple con el mandato parlamentario

por lo menos entendemos que el gobierno ha hecho su parte ha presentado su documento y ahora ese documento es el momento

ya se ha cumplido por lo menos en cuanto a gobiernos se refiere

a nadie se nos escapa su importancia y los inconvenientes que genera la imposición de la prohibición de desarrollar ope por parte de la normativa básica estatal

edo hezkuntzan egindako deialdiak por lo tanto el gobierno vasco también ya ha anunciado dentro de

se comprometía en el acuerdo adoptado en abril de dos mil catorce

estoy de acuerdo yo también que se ha equivocado hoy de debate aquí la iniciativa que hemos presentado hoy aquí va dirigida precisamente a esa aprobación del plan a elaborar el calendario negociado con la representación sindical no va dirigida a entrar

trabajadores ya habrá tiempo después para entrar en ese contenido eso no tocaba hoy aquí estoy completamente de acuerdo

de momento es un borrador porque no se puede afirmar evidentemente que tenemos ya el plan cerrado porque ese plan

se presenta a la mesa sectorial y empieza la negociación y por tanto no podremos hablar de un plan terminado y un plan real hasta que no esté cerrado

y yo en mi intervención les he apelado a la lucha y a la búsqueda de ese acuerdo que creo que es fundamental pero por otro lado a parte del plan hace referencia a la elaboración de ese calendario de ope ese calendario de ope que todavía no conocemos bien que no han negociado ni cerrado con los representantes de los trabajadores y eso es fundamental

ha pasado bastante tiempo en esta legislatura y seguimos sin saber realmente las plazas que van a sacar las plazas que se van

evidencia desde luego una plantilla media de cincuenta coma ocho años que se jubilará en un sesenta y ocho por ciento en el año dos mil treinta

del treinta y tres coma nueve por ciento y el plan detecta este borrador del plan detecta desigualdades de género muy importantes habiendo

de menor categoría y les afecta mucho más la interinidad también recoge que el sesenta coma ocho por ciento de las mujeres que trabajan en la administración general de euskadi lo hacen en puestos inferiores a los que corresponden a su formación tenemos cuatro mil ochocientos ochenta y ocho personas que son funcionarios de carrera

generales de la administración vasca y debe el plan reorganizar de una forma eficaz y eficiente esta estructura para responder a los tres retos prioritarios a corto y medio plazo por tanto yo creo que la enmienda transaccional que hoy vamos a aprobar aquí es importante

este periodo de sesiones el mandato que hoy vamos a aprobar que nos traiga elaborado el plan de empleo de la administración de euskadi

acordado y negociado con los representantes sindicales

del presente y futuro de nuestra administración vasca creo que el esfuerzo merece la pena cumplan de una vez con los mandatos que se aprueban en la cámara respecto de los empleados públicos porque si no en junio estaremos demandando de nuevo

eh bildu si importante es crear empleo y que el gobierno

que ayuden a crear empleo más importante es mantener el empleo existente y creemos que no podemos hablar de un plan de empleo público si no rechazamos las medidas que han ayudado a destruir empleo público

si no el resto de los grupos gaur berriz ere langileen eskaeraren aurka egiten duzue

han esaten zen que elaborara un plan de empleo para la administración vasca

es decir su parte la parte que le correspondía de la propuesta ya se ha realizado entonces en ese sentido entendemos que el mandato ya se ha cumplido otra cosa es que ahora sea el momento

y que se negocie antes de que podamos conocerlo aquí cuál va a

definitivo está claro que acordar no es lo mismo que negociar pero bueno está claro

en el año dos mil diez cuando hubo una bajada del sueldo de los funcionarios del cinco por ciento cuando se eliminó el contrato de relevo

de decisiones por parte del gobierno del partido socialista

que no fueron ni acordadas ni negociadas con la parte

sindical entonces nosotros entendemos que una cosa es la voluntad que es de negociar que se haga todo lo posible por llegar a acuerdos y otra cosa es que sea posible desde luego

en este caso el partido socialista no está en posiciones de dar lecciones a nadie ni de reprochar

y lo que entendemos es que sí que es necesario por lo menos que se lleva a cabo un proceso de negociación